el la enmienda transaccional a los ponentes para que tengais antes de empezar el debate si quereis leer antes e eta guanche minutu baten berrio ekingo diogu

gracias presidenta señorías bueno pues después de este receso continuamos con el debate permítanme

utiliza la técnica dialéctica de dar lecciones al oponente no que está muy bien pues vamos a recordar una quiero compartir con ustedes una anécdota universitaria

en la universidad cuando se pone a veces una pregunta en derecho y el alumno no tiene ni idea pues hombre lógicamente no la deja en blanco entonces se inventa una respuesta es lo que se conoce técnicamente como una inventada es una forma de salir al paso

que puede tener o no relación con aquello de lo que se está discutiendo pero bueno es una inventada a ver si cuela y la verdad es que estoy triste por el tema

más o menos las conozco más o menos las conocía yo estoy encantado de tener un debate sobre todos los temas que han salido aquí hoy estoy encantado de tener un debate

sobre el tema de la reinserción social estoy encantado de tener un debate sobre el tema competencial estoy encantado de tener un debate

qué gobierno puede gestionar mejor una reinserción o puede gestionar estoy perfectamente encantado de verdad si buscan a alguien que rehúya el debate no pregunten por mí de verdad lo que pasa es que ese no era hoy el debate ese no era hoy el debate el debate siento permítanme que les lea brevísimamente en la justificación usted señora gorrotxategi ha dicho no es que en la se habla en la propuesta en la propuesta no se habla de la privatización

el gobierno ha dicho que tiene un borrador de acuerdo con el gobierno central

se dice que ese traspaso reviste una importante complejidad técnica y administrativa yo creo que hasta aquí podríamos estar de acuerdo y que por todo ello

lo que se va a votar luego el pleno del parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en un plazo de veinte días se informe a los grupos parlamentarios de esta cámara

cada uno pues ha venido a hablar de su libro que está muy bien además intentan que luego yo me meta también a hablar de los debates encantado pero hombre en otro momento

era para destacar y sobre todo reforzar la posición institucional de este parlamento era ese el debate y yo encantado de entrar en los otros pero el debate hoy era ese la propuesta bueno de podemos pues al final ha ido pues con el gobierno y ha pactado con el gobierno que efectivamente pues con esto

pues una pequeña victoria parlamentaria porque saca adelante una transacción está bien entiendo que lo hace porque

pero bueno ya ha pactado usted otras veces con este gobierno en temas presupuestarios

y sobre todo me parece huir del verdadero debate que nos reunía aquí hoy

está cada uno que hable de su libro y entonces esto no será un debate

sin más y no habrá un verdadero debate porque ese era el debate el tema de

la señora san josé pues sí me ha la verdad que me ha gustado mucho su intervención la verdad que

de lo que lo hizo el otro día la consejera desde un punto de vista dialéctico parlamentario yo creo que lo ha hecho usted muchísimo mejor ha sacado argumentos la mayoría falaces y tal pero lo ha hecho bien se ha esforzado la mujer y lo ha hecho bien

simplemente ver si es conveniente que el gobierno nos mande información

ha leído un poco más lento y he podido coger casi todo lo que decía pues sí hablaba de enredar confundir embarrar no sé qué y tal oiga yo simplemente le pido al gobierno que nos pase la información simplemente y luego a partir de ahí lo digo sinceramente estos dispuesto a discutir cualquier cosa cualquier cosa

me encanta que me critique y me acuse de todo lo que usted quiera yo cada acusación suya me la pongo como una medalla y además señal de que algo estaré haciendo bien

un grupo como el suyo que todavía no ha condenado la violencia etarra

nosotros no todavía estamos nosotros esperando también que hagan eso

el debate era que este parlamento tiene que ejercer la función de control al gobierno y tiene que exigir ese tipo de información y lo contrario sí que es embarrar e irse

bai bueno en mi intervención yo he dicho que

el debate que se proponía y era traer a esta cámara el debate o la valoración

de transferencia de la competencia en materia penitenciaria pero ay perdón laura es que me

digo que he manifestado que yo compartía el punto de partida pero sin embargo es cierto y tenemos que reconocer que esta propuesta

en un presupuesto ideológico previo que además ha sido transmitido en la intervención también no solamente hoy sino también

no vuela sola sino que tiene un sustento muy concreto

y en base a ese sustento es por lo que hemos considerado introducir otro tipo de valoraciones y presentar una enmienda que además de recoger la propuesta de traer el debate al parlamento recogiera también el modelo se basara en esas resoluciones adoptadas en el pleno monográfico del año pasado porque ciertamente

una subespecie humana que no merece dignidad que no merece reconocimiento y no merece dignidad la privación de libertad es una pena es una pena grave es una pena dura

lo que las instituciones tenemos que garantizar es que la humanidad

no se pierde en el trato a esas personas y que no se ejerce más sufrimiento que el que lleva estrictamente aparejada la pena ni para esas personas ni para sus familias y eso solamente se procura a través de un modelo penitenciario que es en el queremos incidir pues con la ocasión

el hecho mismo de la transferencia y sin más muchas gracias eskerrik asko

reiterada otros no pueden decir lo mismo considera que es una muy buena noticia que se normalicen los cauces del diálogo entre las dos administraciones para continuar con el exitoso camino que se inició en euskadi hace cuarenta años y que se utilice el cauce previsto que no es otro que la comisión mixta de transferencias para resolver esas cuestiones técnicas

nuestro estatuto es claro en ese sentido y por eso es lamentable que se haya cuestionado y se siga cuestionando esta transferencia y que se hayan querido hacer interpretaciones totalmente ajenas a la literalidad de nuestro estatuto de autonomía señora martínez

infames son sus palabras infame es el debate que pretende traer hoy aquí

se hable de lo que se hable usted trae siempre el mismo tema y bueno tengo que decir que los socialistas vascos somos partidarios del acercamiento de

cumplir la ley para buscar que quienes han atentado contra la sociedad se quieran reencontrar con esa sociedad asumiendo su error los socialistas creemos que

sepan que euskadi es lo contrario a lo que quisieron imponer y eso les ayudará a comprender su gran fracaso personal político y ético

la consejera de gobernanza pública y autogobierno la señora garamendi desgranó con detenimiento

el marco normativo que regula la manera de proceder a la hora de abordar el traspaso de una competencia así como

elaborarse y firmarse una vez alcanzado el acuerdo entre partes ahora se está en fase de negociación y la sailburu detalló de forma exhaustiva todos los pasos que se están dando una transferencia es una cosa muy seria y que afecta no solo al conjunto de la sociedad sino laboralmente a muchas personas por lo que hay que hacerlo con cuidado responsabilidad

en el colectivo afectado en el terreno material y personal se trata de transferir el personal de instituciones penitenciarias que se integrarán en la estructura de la administración

con respecto al personal hoy ya trabajan de forma coordinada los funcionarios que dependen de la administración del estado y los que dependen de la administración autonómica

que es así desde el año dos mil once cuando un gobierno entonces socialista en euskadi y socialista en el estado consolidaron un modelo de gestión coordinada en materia sanitaria educativa de orientación laboral de reinserción y gestión de penas que favorece ese objetivo

nuestro sistema de justicia juvenil aun con las marcadas diferencias entre un sistema y otro es una referencia por otra parte el convenio firmado en dos mil once entre la entonces consejera idoia mendia y la secretaria de instituciones

y medidas en medio abierto o alternativas a prisión trabajos en beneficio de la comunidad suspensiones de condena y medidas de seguridad a tal fin se creó el servicio vasco de gestión de penas que fue

que nos ha proporcionado una idea clara de qué podemos y qué debemos hacer para tener éxito en la meta de conseguir que euskadi reduzca su población reclusa

este servicio apuesta decididamente por la reinserción con equipos multidisciplinares que aseguran el cumplimiento de las penas en medio abierto

hemos hecho los deberes y nos hemos ido preparando para recibir esa transferencia por todo lo expuesto nosotros vamos a votar la enmienda transaccional que hemos llegado

grupo elkarrekin podemos izquierda unida muchas gracias por el esfuerzo por intentar acercar posturas

eskerrik asko mahaiburu andrea señor gordillo nosotros no hablamos de nuestro libro

que no sepamos yo entiendo que ustedes

en el estatuto y que su acción política vaya encaminada a frenar el traspaso de competencias y pretender que los demás renunciemos a impulsar y a desarrollar y no desarrollar un calendario pactado llaman a incumplir el estatuto y lo que es lo mismo llaman a incumplir la ley y lo hacen conscientemente

siempre nos van a tener ahí enfrente porque nosotros sí creemos firmemente que el autogobierno en el autogobierno que ese autogobierno significa bienestar para nuestra ciudadanía y alcanzarlo plenamente

y consiguiendo materializar sus traspasos van a ser siempre los pilares básicos de este gobierno y sobre ese principio sobre el que se trabaja con un fin conseguir que se cumplan los compromisos adquiridos y asumidos para completar el autogobierno reconocido en el estatuto de gernika con una forma

clara y ordenada y con unos medios siguiendo un cronograma de negociaciones en relación a dichos traspasos que se ha fijado con la otra parte que es en este caso el gobierno español creo señor

claro y que aquí no hay ningún oscurantismo ni nada por el estilo usted sinceramente

ni por el discurrir de la negociación en el traspaso de las competencias ustedes atacan

y de improvisación dichas negociaciones que es el trabajo de dos equipos el del grupo de trabajo del gobierno vasco y el del gobierno español

de lealtad responsabilidad y seriedad la misma lealtad y la misma responsabilidad con la que y por la que en el momento que corresponda el fruto de dichas negociaciones y de dicho trabajo de dichas reuniones técnicas el acuerdo

mixta de transferencias será remitido a esta cámara para su conocimiento y exactamente con esa misma responsabilidad

es con la que se llevará posteriormente la gestión de la competencia adquirida buscando siempre como le he dicho el buen funcionamiento

y se hará mediante un modelo que se basará precisamente en las propuestas de resolución que han salido de esta cámara

la pasada legislatura que se presentará también a esta cámara y sobre el cual habrá la facilidad para poder llevar a cabo un seguimiento como así se ha acordado en la enmienda transaccional a la que hemos llegado con elkarrekin podemos y este es el momento en el que aprovecho para dar las gracias tanto a la señora gorrotxategi como a la señora san josé para poder alcanzar

decirle que cuando tenga tiempo reflexione y defina la palabra reflexión autocrítica también le añado que se lea el programa hitzeman ese al que he hecho antes alusión

por otro lado señora gorrotxategi la pena de prisión se da por un delito grave

son culpables de asesinato o son cómplices de ello no olvidemos eso

íntegras algo que no se está haciendo así que no nos hable de derechos humanos en este caso eskerrik asko martínez andrea eta amaitzeko

señor gordillo era difícil traer el tema de la

puede escudarse tal vez por cierta ingenuidad pero es que usted también ha entrado en el tema usted ha hablado de la competencia

datos que son incorrectos porque hay sitio en las cárceles vascas

internos en régimen cerrado y que hoy está a la mitad de capacidad

computamos que hay seiscientos ochenta y seis presos de residencia en las tres provincias vascas que están en cárceles del estado y usted lo estima en dos mil pero es que no es cierto son seiscientos ochenta y seis puede fluctuar uno arriba uno abajo y otro tanto

en las cárceles vascas que tendrían derecho a ser llevados a las de arraigo familiar o social en otras partes del estado no hay sobrecarga no hay una falta de capacidad lo que hay es un exceso de catastrofismo por su parte

reivindicaciones corporativas de los funcionarios que entiendo que están en un momento de ansiedad ante el cambio que se va a producir y cuando usted además se enfrenta al tercer sector

se tiende a privatizar ciertos servicios cuando en una propuesta de resolución

lo ponían en valor hace dos años solicitando que se creara una mesa de participación social con la integración del tercer sector que trabaja en la población reclusa

o tal vez no pero nos vamos a ir de aquí sin saber si usted mantiene aquella postura que tenía la señora llanos en aquel monográfico hace dos años es decir cuando decía que no se daban las condiciones para traer la competencia de penitenciario a este país y yo querría saber cuál es su opinión al respecto porque usted reclama transparencia

realmente cuál es su postura hoy en día va a ser su grupo ikusi dut zein den testua ekartzen dena

que continúe con la política de transparencia habría mucho que hablar de esto pero estamos de acuerdo que hay que remitir a la cámara el acuerdo final de esta negociación de la transferencia

de dos mil diecinueve y que se debata en la comisión que corresponda el modelo o el plan que haya que traer

he dicho antes que se podía haber avanzado señora artolazabal se podían haber hecho algunas cosas de aquellas

aprobaron hace un par de años porque se hablaba

y no sé si se han realizado porque se hablaba de crear un órgano coordinador a través del cual se busque el éxito de la ejecución de las penas y medidas implicando a los departamentos de salud educación empleo políticas sociales y seguridad

resolución trece colaborar con los colegios profesionales de abogados y abogadas

diseñar un plan de trabajo para incorporar el respeto a las diversidades de género de capacidades de cultura de idioma del funcionamiento de las prisiones

importante solicitamos al departamento de justicia que realice sin más demora

una evaluación sobre la situación específica de la mujer en centros penitenciarios dotar a las entidades del tercer sector

reforzar los itinerarios de acceso a títulos de formación profesional o a títulos universitarios importante también elaborar un análisis organizativo para dimensionar adecuadamente la plantilla con el fin de establecer un ratio adecuado entre funcionarios y personas presas

no voy a seguir mencionando lo que quedó atrás vamos mirando hacia adelante pero sí me van a permitir que

haciendo una mención y poniendo en valor la resolución octava de aquel pleno monográfico que dice literalmente el parlamento vasco reclama el acercamiento

con arraigo en euskadi a las cárceles de la comunidad autónoma

debemos seguir trabajando ensanchando el apoyo a esta resolución que ahora todos los que vamos a suscribir

buenos días en primer lugar agradecer al grupo proponente en este caso eh bildu
la iniciativa la hora de plantear un debate que para nuestro grupo es fundamental que es

la posición que ocupan en este sentido

en la asunción de responsabilidades para dar respuesta a la situación de covid y a muchas más y también en la cadena de financiación qué posición ocupa que bajo nuestra

por una sencilla razón porque asumiendo la mayoría de las responsabilidades en la respuesta a la situación que es sabido de crisis de pandemia

los municipios el nivel más cercano a la ciudadanía ha sido el que menos recursos ha disfrutado

haga mención a los primeros tiempos de la covid cuando la incertidumbre era la tónica habitual cuando faltaban mascarillas gel hidroalcohólico

a la que recurrían de manera más perentoria era

básicamente por ser los más cercanos y en este sentido como los ayuntamientos se encontraban con unos servicios sociales absolutamente desbordados con unos centros cívicos teniendo que ser cerrados con unas oficinas administrativas teletrabajando eso sí cuando

empezaron a tener eco en el nivel foral o en el nivel autonómico vimos cuál era la respuesta y esta fue básicamente

para que esta no afectara esta caída digo la recaudación no afectara al nivel territorial y por nuestra parte ya en su momento hicimos críticas en este sentido porque considerábamos que dejar sin recursos a la primera línea de acción era un gravísimo error lo planteamos en las juntas lo planteamos en los ayuntamientos donde tenemos representación

a los gobiernos forales no quisieron escuchar mantuvieron su línea y fue la de infrafinanciar local pero esto no viene de ahora es básicamente el sistema financiero que aplica a nivel local y viene básicamente en parte

en las plusvalías que derivan de las acciones en el nivel inmobiliario en el nivel urbanístico ya sea vía

residenciales o en su caso obra pública no se ha revertido

esa concepción respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras viviendas y también con lo que tiene que ver con la vivienda en sí misma como bien de mercado

por desgracia y en ese sentido los ayuntamientos tienen pocas capacidades y pocas herramientas para financiarse más allá

de estas vías nos hemos encontrado también con la tesitura de hacer

al reparto de los fondos europeos y bueno la verdad es que sería en fin

pleno monográfico en el que se pudo plantear resoluciones en este sentido y también

sistema de establecimiento de los proyectos

no hemos sido nosotros y nosotras los únicos que hemos criticado en este sentido la actuación del gobierno vasco sino como ya se decía los vicepresidentes de eudel ya verbalizaron en este caso un alcalde socialista y una alcaldesa de eh bildu verbalizaron

los proyectos que se planteaban desde el gobierno vasco respecto a diferentes realidades municipales como se había incidido en proyectos ligados a las capitales territoriales y se había dejado de lado a otros muchos medianos y pequeños la falta de transparencia en relación con el proceso de definición de estos proyectos y también el escaso papel que había tenido en todo ello un órgano fundamental como en este caso es eudel de hecho yo recuerdo que en la comisión en la que se dio cuenta de la tramitación de los fondos europeos se verbalizó que justo el día siguiente a esa comisión se iba a celebrar una asamblea de eudel en la que se iba a hablar

en esa asamblea de dichos fondos europeos y a la vista de la crítica de

pues parece ser que no tuvieron ese papel que en la enmienda que se plantea debiesen de haber tenido en la definición de los proyectos que en euskadi

a madrid y en este sentido consideramos que tiene que haber una reconsideración por parte de los partidos que sostienen al gobierno y plantear

porque como ya decía en mi primera parte de intervención resulta fundamental que estos dispongan de los recursos necesarios a la vista de que son los primeros

en la línea de acción contra el covid y contra las repercusiones

y a ustedes señorías y también a los grupos

que es importante además que se tenga en esta cámara y creo que es un debate que además tiene la máxima actualidad y sobre todo es un debate del que la ciudadanía se puede beneficiar y los poderes públicos de las distintas ideas que contrastemos nosotros aquí hoy la propuesta esencialmente que ha cambiado un poco después de la transacción a lo que se refiere es a la constitución de un fondo extraordinario

hay que reconocerlo son la administración más cercana al ciudadano y muchas veces es la administración a la que por defecto los ciudadanos acuden en primer término puedan hacer efectivamente frente a necesidades pues nuevas que efectivamente

esa petición de creación de un fondo viene acompañada de una serie de cuestiones también de reformas de la propia administración la digitalización que

y viene acompañada también de dos cuestiones una relativa a la reserva que se establezca una reserva del treinta por ciento de los fondos que se obtengan en su día

de europa precisamente para reservarlos a la gestión de los ayuntamientos y reservarlos también

en la propuesta a través de un proceso efectivamente que sea como se dice ahí pues distinto con una participación etcétera o sea básicamente es

para atender a una serie de necesidades haciendo una reserva específica de una cantidad determinada de unos fondos futuros y luego con un nuevo sistema quizá como se

yo me leo las propuestas aquí pone la devoción entiendo que quiere decir la devolución

lo que sucede es que yo creo que toda propuesta relativa a la alteración y sobre todo a la mejora en la modernización de las administraciones públicas cosa con la que

de lo que es la estructura administrativa y sobre todo un análisis de cómo se va a llevar a cabo luego este tipo

de digamos distribución de los fondos y aplicación de las competencias me explico o sea el debate es de extraordinario interés hombre lo trae bildu que efectivamente

poder institucional en los ayuntamientos esto entiendo que tampoco es casual si lo tuvieran en la diputación y a lo mejor lo traían

es otro debate interesante en el que podemos entrar en otro momento en el tema de la administración pública un debate

socialista que ya parece muy olvidado en un informe por ahí el de las duplicidades

eso lo hemos pasado y tal se han hecho reformas ninguna reforma se ha hecho para evitar las duplicidades existentes entre el gobierno vasco entre las diputaciones forales y entre los ayuntamientos hay que tener en cuenta una cosa la administración no es un fin en sí mismo la administración es un medio para prestar una serie de servicios si la estructura administrativa consume la mayor parte de los recursos económicos que se dedican a ella si es la estructura administrativa como tal la que gasta esos recursos

en la propuesta que nosotros hacemos en primer lugar se reconoce efectivamente el papel que los ayuntamientos han tenido pandemia y se reconoce además positivamente también lo que nosotros proponemos es que se establezca pues hombre un catálogo de buenas prácticas por lo menos ya que a lo mejor una reforma específica y en profundidad de la administración vasca es algo mucho más complicado pero por lo menos que se establezcan unos catálogos de buenas prácticas en las relaciones también que se establecen entre los ayuntamientos las diputaciones forales que al final

de autoridad prácticamente tutelar en materia económica de los ayuntamientos proponemos nosotros también igualmente que sí que se abran vías de financiación extraordinaria

lo único asegurando siempre la coordinación la coordinación y la colaboración entre todas las administraciones no se trata esto de que se haga un reparto lo del ayuntamiento para el ayuntamiento lo de la diputación para la diputación el gobierno el gobierno y que cada uno actúe

el debate que hemos tenido antes sin entrar realmente en la cuestión que se está

con lo cual el efecto es que se duplican estructuras se gasta más pero oiga si la administración es un fin en sí mismo pues se está haciendo bien

para garantizar que los ciudadanos tienen una serie de servicios pues entonces eso es lo que se está haciendo mal por eso nuestra propuesta va encaminada a que se mejoren las vías de coordinación

entre los ayuntamientos esto pasa pasa habitualmente que se producen duplicidades que se producen en ciertos momentos

lía confunde al ciudadano y además tiene un coste específico además yo creo que es muy importante también cuando hablamos de dinero público esto no está en la propuesta pero

se refuercen sobre todo también los controles cuando estamos manejando dinero público

los controles económicos por ejemplo en el último informe que nos ha hecho llegar el tribunal de cuentas por cierto que está la comisión de economía ahora en proceso

catorce ayuntamientos que no han enviado la información que les ha requerido el tribunal de cuentas para auditar sus cuentas simplemente que esto tampoco es una cuestión

de presunción de que pueda haber cualquier tipo de ilegalidad ni mucho menos pero oiga es que

que el parlamento también lanzara un mensaje en este sentido

del control de la ejecución presupuestaria algo muy importante y muchas de las administraciones de esta comunidad autónoma pues

la propuesta que nosotros hacemos reconociendo evidentemente y lo vuelvo a decir el interés que tiene este debate

porque establece unos sistemas de reserva de financiación para los ayuntamientos sin haber procedido a un análisis previo sobre todo de cuál es la situación

es algo que debe salir debe surgir de un informe previo que se haga

los servicios que se quiere prestar a la ciudadanía y cuál es el nivel administrativo que de una forma más eficiente los puede prestar a lo mejor la conclusión es que la mayoría

o a lo mejor la conclusión puede ser que ciertos servicios los debería

pero creemos que eso debe ir precedido de un estudio preliminar y en todo caso es verdad que la situación es acuciante

y por eso nosotros planteamos la propuesta efectivamente que se abran vías de financiación pero buscando también la coordinación entre las administraciones por qué no nos parece que la reserva del treinta por ciento de los fondos europeos esté bien además de por esta razón pues mire es que establecer una reserva sobre todo cuando tampoco sabemos de qué manera se va a articular el tema de los fondos el gobierno central parece que está muy seguro de que va a conseguir una serie de fondos veremos a ver

que lidiar que negociar y sobre todo que presentar propuestas a las instituciones europeas sabe que no solo te lo miran con lupa sino que además luego se ve la ejecución

hay una serie de puntos de momentos hitos que se llama esto en la aquí hay muchos profesores o varios profesores de universidad saben a lo que me refiero

pues te van a pedir cuentas y si no lo cumples a lo mejor tienes que devolver por eso creemos que la reserva específica tampoco es una cuestión que aporte nada oye pues sí pues un titular una discusión o lo que queramos no y luego finalmente la propuesta del gobierno pues hombre es un poco en el hilo de lo que es el grupo que sostiene o los grupos que sostienen al gobierno que sí que lo está haciendo muy bien

nosotros creemos realmente que primero el debate es interesante no obstante la resolución que se propone parte yo creo de un análisis que no es correcto y por eso

o no que han estado en euskadi al pie del cañón durante un larguísimo año día a día ejerciendo sus competencias y superando en ocasiones sus responsabilidades al servicio siempre de la ciudadanía y con la finalidad de dar respuestas y soluciones de forma urgente y coordinada interinstitucionalmente un ayuntamiento efectivamente es la administración pública más cercana a la ciudadanía y a los ayuntamientos vascos les ha tocado

han tenido que tomar medidas económicas fiscales o sociales

unas medidas que han ido dirigidas y aún hoy están orientadas a paliar la grave situación que ha padecido y está padeciendo tanto la ciudadanía como su tejido

los ayuntamientos a lo largo del año dos mil veinte con unos presupuestos no adaptados al estado de alarma y al confinamiento de la población ni tampoco a la emergencia sanitaria

urgente a un incremento considerable del gasto público tanto por incrementos de gasto de personal como en gasto corriente transferencias corrientes y de capital y han tenido que hacer frente efectivamente a un descenso de ingresos presupuestarios

como la que ha provocado la pandemia tanto en los capítulos de ingresos por impuestos directos indirectos como en el capítulo de tasas o los ingresos por transferencias corrientes

a partir del mes de marzo asumieron además de sus responsabilidades competenciales incluso asumieron la puesta en marcha de ayudas o actuaciones por competencias que les correspondía a otras instituciones los indicadores de proximidad

derivaron en la realización de diversas acciones que después de los primeros meses

comenzaron a provocar desajustes presupuestarios en las cuentas locales los ayuntamientos vascos llegaron a crear por ejemplo líneas de subvención locales para complementar

incrementaron ayudas de emergencia social emitieron bonos para adquirir alimentos productos de higiene y limpieza

reforzaron las ayudas para la lucha contra la pobreza energética establecieron medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar crearon líneas propias para ayudar a la contratación de personal para el cuidado y atención de menores o de personas dependientes

refuerzo de líneas de ayudas para la compra de material escolar en el comercio local

para adquirir también ordenadores para hacer frente el confinamiento y a la brecha digital que se estaba planteando con inmediatez

reparto de mascarillas y dotación de productos sanitarios necesarios para los servicios municipales propios para prestar esos servicios con el máximo de garantías sanitarias etcétera etcétera etcétera es decir etcétera de acciones y medidas de lo más diverso y de larga duración que se han ido también adaptando a la evolución de la crisis sanitaria

según sus competencias los ayuntamientos han recibido ayudas de otras instituciones pero también es verdad que han tenido que hacer frente a la implantación de estas medidas

añadiéndose la dificultad de la minoración de esos ingresos municipales que habían previsto para dos mil veinte al reducirse la recaudación por impuestos tasas municipales y precios públicos no han podido ofrecer

esos recursos propios a esta situación municipal difícil y también compleja se sumó la alerta de la brusca caída de la recaudación por tributos concertados de las diputaciones forales lo que conllevó a la necesidad de adoptar medidas preventivas que no llevaran a fin de año económica de las entidades locales las adaptaciones presupuestarias de los ayuntamientos a las acciones y medidas y la coordinación interinstitucional para mejorar los mecanismos competenciales fiscales y financieros de los ayuntamientos han sido factores claves para evitar

para las situaciones que estaba provocando la pandemia hasta aquí el diagnóstico que creo que compartiría toda la cámara pero esta iniciativa de euskal herria bildu ya fue registrada

que había promovido el debate entre las diversas instituciones vascas como ayuntamientos y juntas generales de los tres territorios históricos habiendo fracasado en muchas de ellas y ahora

en coherencia con la posición que hemos mantenido en otras instituciones y que se la voy a explicar

nos han situado en otro escenario un escenario diferente al de los primeros meses de la pandemia en euskadi un escenario más coordinado y colaborativo interinstitucionalmente

que se sustenta en el riesgo compartido con unos presupuestos para dos mil veintiuno aprobados o en camino de aprobarse y adaptado o camino de adaptarse

nuevas condiciones financieras y fiscales que provienen de acuerdos sustanciales para los ayuntamientos tanto para el año dos mil veinte como para este año dos mil veintiuno y que configuran todo ello un marco económico y presupuestario excepcional

en este contexto de crisis económica y sanitaria mediante el acuerdo de la comisión mixta del concierto económico de treinta de septiembre del año pasado se acordaron objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el periodo dos mil veinte y dos mil veintiuno

objetivos específicos de déficit y deuda pública para el gobierno vasco y hete aquí que también objetivos de déficit conjuntos para las diputaciones forales y esto es muy importante y además ha sido muy razonable que el objetivo de déficit aprobado para las diputaciones forales

porque este es un elemento fundamental para ampliar la capacidad económica municipal el consejo de ministros

decidió como medida extraordinaria suspender las reglas fiscales en dos mil veinte y dos mil veintiuno coincidiendo además esta decisión con la activación por parte de la comisión europea

con el objetivo de dotar a las administraciones públicas de la flexibilidad necesaria para luchar

supone el abandono de la senda de estabilidad de forma que los objetivos de déficit y deuda aprobados por las instituciones vascas deben ser tomados como tasas de referencia que permitan el funcionamiento presupuestario ordinario en los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno y de esto son partícipes los ayuntamientos vascos

vasco de finanzas públicas acordó el quince de octubre de dos mil veinte distribuir los objetivos de déficit de las diputaciones forales entre los territorios en función

de ahí que las diputaciones forales hayan establecido a través de decretos forales norma

de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales y que los presupuestos municipales para dos mil veintiuno estén recogiendo todos los mecanismos y herramientas económicas y financieras en estas nuevas circunstancias para realizar las acciones que los ayuntamientos consideren oportunas en la lucha contra las consecuencias económicas y sociales que ha provocado la pandemia en sus municipios las diputaciones forales han elaborado y presentado en las juntas generales de su territorio como digo decretos forales norma de medidas financieras

se aplican a las entidades locales y son prorrogables para el año dos mil veintiuno por tanto en cuanto a las medidas económicas y financieras

creo que está todo debatido todo sentenciado porque ya son

se ha acordado en los consejos territoriales de finanza de los tres territorios históricos

y en cuanto a la iniciativa al último punto sobre los fondos europeos

una enmienda que se corresponde literal con la resolución número veintitrés del pleno monográfico de dieciséis de noviembre pleno monográfico sobre fondos

y ahí se establece cuál va a ser la relación de los ayuntamientos con esos fondos europeos en euskadi el próximo cuatro de marzo está establecida por eudel una sesión informativa sobre los fondos next generation iu

se va a tratar asuntos como cómo puede un ayuntamiento acceder a esta oportunidad para financiar sus proyectos qué convocatorias habrá cómo articular estos presupuestos adicionales cuándo se conocerá si un proyecto concreto puede financiarse con fondos

es decir unas cuantas dudas que en trazo grueso pueden conllevar a especificidades y resoluciones mucho más concretas

yo sí quería decirles esto de declarar un fondo con el treinta por ciento para los ayuntamientos

entre instituciones no va por ahí el reparto el reparto va en función de los componentes y de los proyectos que apruebe la comisión europea pero no porque sea un ayuntamiento no porque sea una cantidad la que nos va a ofrecer no nos dan un dinero y luego distribuimos no no no el dinero viene de la mano de cada proyecto
o cada componente que se va a financiar nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

por enmarcar bien el debate que creo que en algunas de las justificaciones sobre todo en la justificación de la iniciativa original se establecía una especie

que no consideramos que sea oportuna tenemos que dejar bien claro que los fondos vinculados a iniciativa next generation no van dirigidos exclusivamente

en el debate yo creo que todos los que estamos participando tomando parte en él tenemos claro en este sentido tres son van a ser las vías por las que nuestros ayuntamientos

la primera mediante convocatorias directamente gestionadas por el gobierno vasco y las diputaciones la segunda beneficiándose directamente de inversiones previstas por gobiernos y diputaciones y en tercer lugar la vía directa con el estado y lo que los dos grupos sostenemos

y que puedan llegar hasta los ayuntamientos eta hori esanda zure

iristea hay una idea fundamental que queremos destacar nadie puede asegurar nadie puede garantizar

esto no es una bolsa que llegue cuando llegue es otra cuestión que tenemos que tener cuenta y que se pueda repartir en base a unos porcentajes

que no va a ser así y que no puede ser así o hay proyectos en las líneas de actuación aprobadas desde europa o no habrá fondos hemos hablado de esto en bastantes ocasiones y desconocemos cuál va a ser la cuantía final de esos fondos y el ámbito temporal que tendrán

y lo estamos repitiendo todos los días con sailburu azpiazu se está desacreditando diciéndolo pero bueno seguimos con iniciativas en este orden udaleko kaudimen ekonomikoa bermatzeaz

con matices supone incorporar la enmienda de adición del grupo elkarrekin podemos

decirle señor soto y señor iriarte que estamos totalmente en desacuerdo como ustedes saben

y la financiación de las instituciones vascas gobierno vasco diputaciones forales y ayuntamientos responde al principio de riesgo compartido si nos va bien si tenemos buena recaudación

institucionales nos vemos beneficiados y si la recaudación va mal como ha sido el caso como es el caso nos va mal a todos y a todas las instituciones

este es el sistema que está actualmente en vigor este es nuestro sistema si ustedes tienen un modelo alternativo

hasta entonces con el actual con el que tenemos en vigor tenemos que funcionar

en ejercicios con recaudación superior a la prevista que los ha habido y no estoy hablando de hace

la liquidación de los fondos forales de financiación ha sido positiva positiva en esos años nadie pide que los incrementos en los fondos se los queden otros nadie nadie pero cuando la recaudación no alcanza los objetivos previstos algunos grupos

que del agujero se responsabilice otro y oh qué casualidad siempre en beneficio del nivel institucional en el que tengo responsabilidades

como están los alcaldes del partido socialista como están los alcaldes y alcaldesas del partido nacionalista vasco

y sentados ahí hasta ahora había visto en años en los que no se alcanzaba la recaudación

ese tipo de iniciativas pero ustedes han dado un paso más que pague otro que pague el último en este caso el gobierno que ya saben perfectamente qué pensamos de esto

han adoptado sus decisiones han debatido y rechazado

planteando las mismas cuestiones con respecto a la enmienda del grupo popular ciudadanos

a ver aquí hay un punto de partida para mí fundamental yo quiero pensar pero puedo equivocarme por lo visto que estamos todos y todas de acuerdo en que los ayuntamientos son mayores de edad

yo desde luego así lo pienso y así lo creo y así lo defiendo desde luego señor gordillo si los ayuntamientos precisan de elaborar un catálogo buenas prácticas lo harán y si necesitan la cooperación de otras instituciones

pero sin que ellos lo soliciten no creo que tenga que ser esta cámara quien le diga al gobierno que haga un catálogo de buenas prácticas para que nuestros ayuntamientos sigan eh a eso me refería de la mayoría de edad solicitan además de vías de financiación extraordinarias por parte del gobierno y diputaciones para los ayuntamientos con más dificultades y

esas vías en el caso de las diputaciones forales existen otra cosa es que luego cada ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal decida sumarse a ellas o no

y lo hagan o no pero existir existen bien

interinstitucional pues sí sí no tenemos ningún problema

respetando evidentemente las normas de juego de cada uno y
esta es mi primera intervención continuaremos en la segunda eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna

señor gordillo sobre el entramado institucional y la revisión y el duplicidad me hacía gracia yo participe en el dos mil doce creo en aquella comisión

sabe qué comentamos en aquella ocasión sobre una gran duplicidad que existía en nuestro municipio en tolosa

sí sí tremenda duplicidad espero que se vaya cuanto antes bueno

es que ha habido un montón de gastos porque en su transacción pone que las vías de financiación que sean de su competencia claro

muchos gastos que están incluidos que no son competencia municipal pero que las han hecho entonces lo que pedíamos es que

de este dinero y luego vale que no entiendo mi letra pero bueno también sobre los fondos europeos ya que le voy a responder a la señora corcuera y al señor atutxa pues ya

la estrategia de eh bildu pero si estamos de acuerdo en el diagnóstico por qué no podemos llegar a un acuerdo porque en el diagnóstico yo estaba totalmente de acuerdo con lo que usted decía en los

pero luego he visto que habla de estrategia

no es estrategia es necesidad que existe por parte de los ayuntamientos

y parte del equipo de gobierno entiendo que somos conocedores de qué ajuste tienen el presupuesto de qué poca capacidad de inversión tienen si no es propia ninguna y la propia viene por vía urbanismo y ya vemos cómo ha acabado todo eso

sobre el reparto de los proyectos ya evidentemente sí no no es que el treinta por ciento sí el treinta por ciento no

hablar sobre la cantidad de proyectos es que el primer borrador recuerdo que no se habló

asumiendo el criterio de corresponsabilidad que efectivamente rige al entramado institucional

de la pandemia cuando peor lo estábamos pasando fueron los ayuntamientos quienes dispusieron de todas esas medidas que se han enumerado aquí es decir que los ayuntamientos fueron quienes

y luego asumir que ante la pérdida de recursos la pérdida tenía que ser repartida

la solución fundamental de la responsabilidad de dar respuesta a la crisis fue ejercida por parte de los ayuntamientos el principio de corresponsabilidad deberá de exigir que las instituciones que no han dado tanta respuesta a esa crisis apoyen al nivel institucional

el nivel municipal luego con respecto a los fondos europeos se hablaba de las vías

para el acceso a proyectos y efectivamente va a existir la vía de acceso por parte de los ayuntamientos a programas

por convocatoria pero luego también hay inversiones muy concretas que van a recibir recursos directa y la crítica fundamental respecto al desequilibrio territorial es que esos proyectos que sí son muy concretos y que van a recibir inversiones

muy concretos fundamentalmente las capitales que coincide que es justo con quienes sí el gobierno vasco ha tenido contacto y reuniones para definir cuáles son los proyectos que se envían

medianos pequeños en su momento hubo críticas tanto en la comisión de economía como en el propio pleno monográfico al que ustedes se referían

o estaba siguiendo para definir esos proyectos con el nivel municipal y la falta de contacto con eudel eso fue una evidencia

que marcó que el gobierno vasco tenía que incidir en esa coordinación con el nivel institucional

es decir con el organismo que este es eudel pero esa resolución de la que hablan

de envío de los proyectos al gobierno central

que era el documento que se ha de enviar con los ciento ochenta y ocho proyectos a dos semanas vista

para abordar otras nuevas iniciativas no contempladas en ese borrador de documento que

el veintiocho de diciembre no es creíble no es creíble por tanto hubo críticas además muy manifiestas por parte de alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos políticos y también incluso

por ciertos representantes de los gobiernos forales y en este sentido no asumir

una falta de organización y de previsión y de transparencia

que no se ajusta a la realidad y efectivamente sí que es cierto que este debate pese a que se enmarca en la realidad que vivimos ahora mismo del covid y de sus consecuencias

que requeriría una reflexión mucho más profunda que aquí desde luego no hay visos de tenerla

con la financiación del nivel municipal en su conjunto y en su generalidad no que ya ha habido algunas intervenciones de diferentes portavoces

la falta de recursos propios para financiarse y básicamente los únicos elementos ligados al urbanismo que permiten disponer de recursos propios en este sentido y

ligados que están a lo que a nivel foral se decía respecto a su financiación y en este sentido sí que es cierto que se requiere una reflexión en este sentido pero yo creo que el cariz

va en línea de reivindicar un papel más prioritario a nivel municipal

en su nivel financiero como en su primacía a la hora de respuesta en los momentos de crisis económica y que cuando hay una crisis económica lo primero que se haga no sea reducir

municipales del ejercicio dos mil veinte y además sin ni siquiera tener contacto con la mayor parte de los ayuntamientos

en poner en primera línea a nivel municipal como respuesta a las situaciones de crisis
y que se han vivido en el pasado eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

no iba a intervenir en este segundo turno me parecía que las posiciones estaban claras pero por las alusiones no por las alusiones bueno vamos a ver yo creo que el debate este es de interés si el grupo lo ha repetido y tal

parece que he sido el único que me reivindico aquí como el defensor del parlamento pues hombre pues sí pues los grupos de la oposición presentan iniciativas

a defender al gobierno en este caso y a atacarlas o intentar rehacerlas reconstruirlas deconstruirlas etcétera pues

ya lo sabemos pero sí creo que es un debate de interés el analizar de qué manera mejor se pueden coordinar las instituciones nuestras vascas pues locales en este caso forales y también autonómicas el gobierno vasco yo

yo sí creo que elaborar por ejemplo un catálogo de buenas prácticas facilitar todo tipo de información administrativa etcétera y poner a disposición

luego tendrá su responsabilidad política jurídica etcétera pero hombre yo creo que facilitar

yo qué sé es que a mí me preocupa el ciudadano es decir a mí que la trifulca esta entre las duplicidades a veces que pueda haber

el que está en medio es el ciudadano por eso yo creo yo pensaba

simpatía intelectual pero veo que no y yo pensaba que le iba a parecer una cosa bien positiva

y no olvidemos una cosa que es que todo esto es para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y que el ciudadano esté en medio de que si ahora no sé qué de esta administración está enfadada con el

foral no me hace caso que no sé qué que el otro y que existan mecanismos de control yo creo que cada vez más de coordinación quiero decir cada vez más intensos que respondan a la finalidad de todo esto que es precisamente eso que es precisamente mejorar el servicio que se da a los ciudadanos

que por lo demás me ha parecido interesante en casi todas sus posiciones y yo creo que es un debate que debemos traer a esta cámara quizá a través de un pleno monográfico el tema de la estructura territorial de nuestra tierra no bueno aquí se decía que la mayor duplicidad es el cuartel de la guardia civil bueno aparte el exabrupto y tal para buscar el titular que sí hace gracia y tal a su bancada pero hombre

analizar pues cómo es el reparto competencial dentro de una estructura territorial

un debate interesante yo creo que es un debate que podemos traer a esta cámara

el gobierno o los grupos que lo apoyan simplemente lo desactiven y al final

no hagamos un contraste de ideas que pueden ser beneficiosas para la ciudadanía muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias presidenta bueno vamos a ver yo que me declaro además municipalista por convicción y además con devoción

de mi vida política sí quisiera señalar que aquí parece que pasamos de puntillas sobre lo que no nos interesa

que está muy bien el debate que está muy bien tal vamos a ser serios traer este debate aquí a esta cámara hoy supone

porque no es aquí donde se toma la decisión de la financiación de los municipios vascos que el modelo ya está establecido y claro luego empezamos ya con el debate del modelo que parece que es aquí lo que interesa el debate del modelo que al final señor iriarte esto del debate del modelo es una milonga

porque el modelo ya está establecido ya está aprobado legalmente de qué estamos hablando entonces y nos vamos a la demagogia y al populismo

yo me olvido de que hay leyes y oiga venga un fondo para los ayuntamientos porque los malos sean esa bancada pues no

porque hemos estado muy al pie del cañón de lo que pasaba con los ayuntamientos vascos durante este dos mil veinte y porque es verdad que dieron la primera digamos palada a la hora de remar contra el covid pero también han recibido ayudas y luego se han ido poniendo medidas con ese modelo de financiación municipal que tenemos que han supuesto

entre instituciones pero que la política ha sabido resolver la política ha sabido resolver y allá donde había un incendio hubo un acuerdo y un acuerdo además muy positivo para los ayuntamientos en dos mil veinte y para dos mil veintiuno de manera que se aumentaba su capacidad digamos económica

quedarse con los remanentes y acudir a crédito situación excepcional solución excepcional

eso no se hacía antes porque las reglas del pacto de estabilidad es lo que tiene teníamos unas reglas fiscales ahora no

y lo que hacen los ayuntamientos vascos es aprovechar esa mayor capacidad económica que tienen para solventar esas medidas esos desajustes presupuestarios que han provocado

eso es demagogia y populismo cuando uno quiere pasar de refilón por la historia

de capitales grandes ciudades con pequeños ayuntamientos

todos los ayuntamientos de euskadi todos los que así lo han querido están representados en eudel todos allí tienen su asamblea allí tienen sus órganos de coordinación y de ejecución de políticas todos tienen esa posibilidad

no es verdad no es verdad yo comprendo que le duela lo de tolosa oiga pero es que qué le vamos a hacer pues mire para unos donostiarras pues igual es mejor pero como no quiero entrar

pues me parece a mí que hay que decir las cosas con calidad y con rigor

todos hoy disponen están bajo el marco legal de la ley de entidades locales del país vasco de dos mil dieciséis cosa que no tenían yo podía haber defendido algunas de sus estrategias o políticas si me hubiese dice dicho esto en el dos mil catorce en el dos mil trece

con la crisis del dos mil ocho claro que se lo hubiera defendido oiga pero con una ley de entidades locales del país vasco

a qué ayuntamientos menores de edad nos estamos dirigiendo porque no hay ninguno ninguno todos tienen su marco legal hablaba alguien del informe de duplicidades creo que el señor gordillo

y la ley de entidades locales es del dos mil dieciséis por lo tanto no encajan ya están superados determinados debates

quizás superados y creo que merece la pena decir que sí se han dado situaciones excepcionales en el marco financiero y en el modelo financiero que teníamos tanto los ayuntamientos vascos como las diputaciones forales como en la comisión mixta del concierto económico

el consejo vasco del doce de febrero que ya ha hecho las liquidaciones definitivas y que ha podido solventar en cierta manera también esas posibilidades

a las capacidades y medidas que quieren implantar pues me parece que eso

no se puede obviar porque entonces estamos jugando a otro juego que es el de la demagogia y el populismo vuelvo a reconocer dar las gracias a los ayuntamientos

del día a día desde el primer momento de la declaración del estado de alarma y del confinamiento hasta el día de hoy mucho ánimo mucha suerte muchos aciertos en la gestión que les queda por cumplir gracias

señor gordillo decía que a los grupos del gobierno nos molestan un poco los o nos sentimos molestos cuando nos presentan este tipo de iniciativas no es así usted me comprenderá

explicando lo mismo y ve que quien tiene en frente sigue erre que erre sin querer aprender entender o compartir pues uno ya llega un momento en el que dice mire hasta aquí hemos llegado señor iriarte nos hablaba de que hay una cuestión de necesidad y de sensibilidad

la que pueden tener las diputaciones forales de contar con más recursos en estos momentos de las políticas que han tenido que dejar de hacer por la situación en la que nos encontrábamos

la necesidad que puede tener en estos momentos porque en esta cámara claro pedimos más en educación más en sanidad más en todo más en todo a este gobierno

y la oposición ustedes en este caso piden lo mismo más más más más y en los ayuntamientos también más más más y aquí la suma tiene que dar cien

para diputaciones y para ayuntamientos no puede dar ciento cincuenta y ustedes con lo que piden de los ayuntamientos con lo que piden en las juntas generales y con lo que piden en esta esta cámara

y no puede ser no puede ser no puede ser decía que no es una cuestión de donde gobierna euskal herria bildu bueno voy a recordarle cierta liquidación del fondo foral de financiación municipal

en esa liquidación mejor dicho en la reintegración de las cantidades

necesidad mucha pero sensibilidad poca si no me equivoco

de la financiación de las competencias municipales creo que hay un estudio derivado

se estudia cuál era la el nivel de financiación de las distintas instituciones que

y decía lo que decía sí que está claro que estamos ante una situación

se han articulado medidas de financiación extraordinarias la capacidad de endeudamiento de las diputaciones pasar una parte a los ayuntamientos de cada territorio eso es una medida extraordinaria derivada de otras medidas también extraordinarias que

yo para finalizar porque creo que esta cuestión

el papel de todos los alcaldes y alcaldesas concejales y concejalas que han estado y están afrontando problemas afrontando problemas

gracias señora presidenta eskerrik asko presidente andrea bueno en primer lugar agradecer a las personas que nos acompañan en la tribuna del parlamento vasco en este interesante debate y esperemos bueno pues que podamos empujar algo por ayudar

en la medida de lo posible la iniciativa que presentamos por parte del grupo popular ciudadanos entendemos que es una cuestión de dignidad de justicia social y de solidaridad

con una enfermedad mental y que su situación

se ha visto agravada desde que en marzo del año pasado en marzo de dos mil veinte se cambiaron los criterios en lanbide y se les denegaba

con enfermedad que estaban en pisos comunitarios esto se debió a un cambio de criterio hasta entonces estas personas percibían la rgi hay que señalar que estas personas con enfermedad mental percibían la rgi porque

forales un recurso residencial y

no posibilidad de acceder a un recurso de estas características pues la solución entendemos que era una solución transitoria pero una solución era

tener un alojamiento en viviendas comunitarias como digo al cambiarse el criterio en relación a la concesión de la rgi en relación a estas personas

en marzo del año pasado se aplica estrictamente y dentro de las excepciones ya no se les contempla

y por lo tanto dentro de esas excepciones que se hacía a dos personas o dos convivientes

por vivienda por alojamiento sea privado o colectivo pues ya no se les admite y se les deniega la

como están contempladas en el decreto que desarrolla la renta de garantía de ingresos del año dos mil diez son los pisos de acogida los centros residenciales para personas

víctimas de violencia de género por lo tanto repetimos estas personas ante la falta de recursos públicos por parte de las instituciones forales

comunitarios en el que estaban viviendo y gracias a que recibían una ayuda como es

recibirla desde marzo del año pasado por este cambio de criterio al que he hecho referencia yo creo que nos tenemos que hacer todos cargo y sobre todo en un gobierno

de cuál puede ser la situación de estas personas con enfermedad mental que se han visto de la noche a la mañana en la calle y en una situación total de desamparo yo creo que merecen un mínimo de atención y desde luego un esfuerzo por parte del gobierno vasco en este caso para encontrar una solución que creo que es de justicia

momentos está claro que este colectivo lleva siendo abandonado por parte de las instituciones no solo forales sino por parte del gobierno vasco

insuficientes los recursos de las instituciones forales los recursos públicos por otra parte la solución del gobierno vasco desinstitucionalizar a estas personas

con una medicación y parece que esa es la solución esa no es la solución estas personas hay que obviamente darles más alternativas sobre todo

que presentan las personas con enfermedad mental decía que el gobierno vasco no ha hecho sus deberes no ha hecho sus deberes en relación a como decía a la política o el criterio que sigue se sigue desinstitucionalización de estas personas dejándolas prácticamente con una medicación la falta

los convenios de salud mental son absolutamente insuficientes y no dan cobertura a las necesidades que en este momento pueden tenerse en este ámbito

del gobierno vasco también en la aprobación del decreto de cartera de servicios sociosanitarios que como no está aprobado no hay servicios y servicios que se puedan destinar y dan respuesta como digo a las necesidades que tienen estas personas por eso presentamos esta iniciativa creemos que es como digo una cuestión de justicia una cuestión de sensibilidad

atención por estar en una situación de especial vulnerabilidad que además se ha agravado una vez que se les ha denegado como digo estas ayudas sociales nosotros siempre hemos defendido

de la ley de garantía de ingresos y para esto están las prestaciones económicas previstas en esta ley para que estén las personas que realmente lo necesitan y las personas

que tenían una solución con la percepción de esta ayuda que les permitía estar en alojamientos y en viviendas comunitarias

era la única alternativa que tenían y por lo tanto al quitarles la única alternativa que tenían pues

de absoluto abandono por eso pedíamos y pedimos

y también al grupo eh bildu que van a apoyar la iniciativa y

la iniciativa y la sensibilidad hacia esta cuestión bueno pues no así lo han entendido los grupos que apoyan el gobierno

que no hayan entendido que es necesario buscar una solución de manera urgente e inmediata a estas personas y a la situación de estas personas con enfermedad mental

para dar respuesta a las personas con enfermedad mental excluidas del cobro de la rgi por vivir en viviendas comunitarias de forma que puedan

creemos como decía que es necesario modificar la normativa de la renta de garantía de ingresos esta es

de este gobierno del gobierno del señor urkullu la pasada legislatura

de investidura el lehendakari nos decía que en el ámbito y la propia consejera de asuntos sociales que además está presente en este debate que los dos

en cuanto a normativas a aprobar era impulsar la modificación de la normativa de la renta de garantía de ingresos y una reforma

esta legislatura también pues estos son los compromisos que ha adquirido este gobierno por eso reclamamos ya de una vez por todas

para efectivamente configurar un sistema justo y que en el sistema estén realmente las personas que tienen que estar y en este caso creo que es de justicia

modifica las normativas en relación a determinadas materias no entendemos la pasividad

en relación a esta cuestión

pues hay que darle también al gobierno vasco otro tirón de orejas en relación

con enfermedad mental en los convenios como decía anteriormente de gasto sociosanitario el caso más sangrante es el de álava el convenio existente con álava

a una deuda con unas importantes cantidades

acumulando a lo largo de los años

suscrito una enmienda de transacción con el grupo elkarrekin podemos al que agradezco bueno pues su generosidad y su disponibilidad a dar solución a este

tengo que decir que en juntas generales fue posible un acuerdo del grupo elkarrekin podemos eh bildu y partido popular en este sentido por lo menos en la votación nos votaron nuestra propuesta original y una vez más quedó en evidencia

obviamente que no ha habido ninguna sensibilidad por parte de porque

hacia esta cuestión hemos incorporado a petición del grupo elkarrekin podemos

cinco barra dos mil diecisiete relativa al compromiso del servicio vasco de empleo de publicar los criterios de tramitación de la renta de garantía de ingresos en relación a varias

tiene que cumplir bueno en definitiva creo que como decía anteriormente estamos hablando de una cuestión de justicia de solidaridad de dignidad y que merece una especial atención por parte de este gobierno y bueno nosotros lo

y por eso decidimos plantear una iniciativa para debate en esta cámara yo quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que dan una solución a estas personas con enfermedad mental que se ven abocadas a cobrar

porque no tienen otro tipo de recursos y ya si estas personas que no tienen otro tipo de recursos encima les dejamos sin la única alternativa yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo todos nos tenemos que hacer cargo en la situación en la que se pueden encontrar y en ese sentido un poco de sensibilidad a los grupos que apoyan al gobierno si además se erigen en un gobierno de un carácter tan social como el que siempre nos predican

buenas nuevamente atendamos al fundamento principal de la iniciativa

y a las diputaciones forales a que articulen de forma urgente una solución para dar respuesta a las personas con enfermedad mental excluidas del cobro de la rgi

en viviendas comunitarias de forma que puedan empezar a cobrar las prestaciones económicas necesarias de manera inmediata nos cuesta creer ya se ha dicho que nos cuesta creer que ante una petición tan concreta tan específica y tan de sentido común

político que siempre se ha referido a la rgi como un derecho subjetivo y no como una ayuda

considera que es absolutamente improcedente establecer requisitos o interpretar los mismos de forma que limiten esta prestación tales como la que hoy

que la enmienda de los partidos que sostienen al gobierno hable de estudiar la oportunidad del cambio de hecho lo dicen así textualmente estudiar la oportunidad nos parece sinceramente un brindis al sol parece evidente la necesidad de su revisión y el eufemismo utilizado

redactar una enmienda y entendemos que para no pillarse los dedos ante algo que es de cajón

el elemento de la oportunidad de la medida

entender cuando se habla de estudiar la oportunidad quién define dicha oportunidad si

a los recursos disponibles para poder hacer este cambio en fin cómo se mide el cumplimiento de este derecho subjetivo en base a la oportunidad

cómo es necesario abordar la oportunidad de esa modificación y en base a qué concretamente se tiene que abordar esa oportunidad ya digo que y se ha explicado anteriormente que esta pnl responde a la situación que se está dando de falta de cobertura de la rgi en personas con enfermedades mentales

como pisos tutelados en el marco de itinerarios de inclusión por lo general

carecen de condición de plaza conveniada o pública que por cierto que esto sea así también es bastante cuestionable

ya que si nos encontrábamos ante una vivienda comunitaria reconocida como servicio conveniado con la diputación desde acción social se suele certificar la excepcionalidad de dicha unidad convivencial

pero repito ante la excepcionalidad es decir que acción social determina que existe una excepcionalidad

en pisos comunitarios conveniados con la diputación en aquellos que no sea así no se admite el acceso a la rgi por parte de los usuarios y las usuarias lo cual nos parece muy grave

ser modificado la propuesta original del partido popular ciudadanos que luego hemos transaccionado ya digo que nos parece muy concreta y perfectamente asumible y razonable aunque también es verdad y no podemos dejarlo pasar que la reflexión en torno a la rgi y las problemáticas que a día de hoy tiene

o reducirse a casuísticas de exclusión concretas creemos que la reflexión debe ser mucho más profunda de ahí la necesidad de que cuanto antes

hacemos este acercamiento al trasfondo de la cuestión es decir a la necesidad de la revisión

es verdad que en esos casos y bueno pues en este parlamento hemos tenido oportunidad de ver esos debates

y ciudadanos y nosotros y nosotras nos solemos ir alejando cada vez más pero en cualquier caso hay que reconocer que en una cuestión tan concreta que hayamos sido capaces de encontrarnos la voluntad de acuerdo que tenemos ambas fuerzas políticas para dar solución a un problema tan evidente y tan claro y desde luego denota en fin la falta

partidos que sostienen al gobierno para dar respuesta a una situación ya digo tan evidente y tan concreta más allá digo de las reflexiones generales que en torno a la modificación de la rgi tendremos ocasión de hacer y que es necesario hacer llegado el momento y que probablemente llegados a ese punto pues haya cuestiones que nos separen

han firmado esta iniciativa pero a la vista también de la enmienda que han presentado los grupos que sostienen al gobierno

a nosotros y a nosotras no podemos olvidar

puesto que no pueden acceder a ella la alta burocratización el endurecimiento de los requisitos de acceso la obsesión por el control y la persecución de un fraude casi inexistente

con situaciones vitales desesperadas no podemos olvidar el momento de emergencia económica que vivimos el aumento de las diferencias en renta que se han agudizado los últimos

en estos momentos de hecho la falta de uso y ambición en lo que respecta a la rgi en este momento de pandemia se corresponde precisamente a lo que mencionaba

en la consideración que hacen ustedes y nosotros y nosotras respecto a la naturaleza de dicha prestación nosotros y nosotras lo consideramos ya digo un derecho subjetivo y así fue considerado en su momento y no una ayuda social por un desempleo

del elemento de la empleabilidad es un derecho subjetivo una herramienta fundamental contra la pobreza y la exclusión social qué mejor oportunidad de hacer muestra del autogobierno de euskadi que ir más allá en el escudo social desplegado para hacer frente a la pandemia y en este caso hacer uso de un recurso tan importante como como es el de la rgi no voy a entrar ahora

de mencionar en su caso y si no tendremos que hacerlo llegado el momento

de esta cámara en referencia a las modificaciones y necesidades que hace falta

desvincular el acceso a la garantía de ingresos del empleo y los servicios sociales

indispensable para tener un mejor sistema de protección social eliminar gran parte

mediante la simplificación de esta en fin cuestiones que ya

encima de la mesa en esta en cualquier caso ya digo nos resulta

llegar a un acuerdo con los partidos que sostienen al gobierno y en cualquier caso

se resume en dirimir la oportunidad de la modificación para hacer frente a una situación tan dramática espero que dicha oportunidad

cuanto antes que esa oportunidad se resuelva cuanto antes y si no

sí gracias presidenta hoy el grupo

mental y parte de la premisa de que lanbide

la primavera pasada a personas con enfermedad mental que residen en viviendas comunitarias sin embargo a nuestro juicio este planteamiento no es correcto y eso porque lanbide no establece criterios de concesión

de qué tipo de enfermedad tenga una persona o no no pregunta si tiene una discapacidad si tiene una enfermedad

lo que sí establece la normativa vigente de la renta de garantía de ingresos son criterios de tipología de alojamiento

y en función de ello cuentan con la autorización correspondiente como alojamiento comunitario y se deniega a aquellos alojamientos que no cumplen

urgente y se plantea como si fuera una situación que se ha dado en toda la comunidad autónoma vasca cuando en realidad estamos hablando de un caso que se ha dado en álava exclusivamente no existiendo ningún caso

en un alojamiento concreto el grupo popular hizo una denuncia pública el catorce de diciembre del año pasado en las juntas de álava y dos meses más tarde

pero en realidad esta iniciativa tiene que ver con los alojamientos colectivos no con las personas con enfermedad mental

y dice que a los efectos de esta ley se entiende por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia

de forma independiente no sometidas a autoridad o régimen común y también la reconoce

independiente por las unidades de convivencia señaladas en el artículo anterior de los marcos físicos de residencia colectiva que se determinen

y en esta determinación reglamentaria el decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez

a efectos de cobro de más de dos prestaciones tiene que cumplir los requisitos para ser considerado centro de acogida temporal es decir no sirve

los centros residenciales o de acogida de carácter permanente estos requisitos son y se hace referencia a los centros sean del tipo recogido bien sean pisos de acogida centros de residencia residenciales para personas en situación de exclusión y marginación o centros residenciales para mujeres víctimas de violencia

y otros servicios residenciales para mujeres y además se exige

estén inscritos dentro del registro foral de servicios sociales

e inspección de los servicios sociales de la comunidad autónoma vasca en el caso de los alojamientos para personas con enfermedad mental

de que según el artículo veintidós de la ley de servicios sociales no están entre los recogidos por la normativa vigente el problema es que el ayuntamiento devuelve

pero eso no quiere decir que lo sean a efectos de renta de garantía de ingresos lo que se ha empezado a revisar por lanbide hace un año

que hasta el momento no se había llevado a cabo es decir no ha cambiado los criterios o los requisitos a exigir siguen siendo los mismos

no se había comprobado ese cumplimiento

y en aquellos sitios no registrados se ha denegado

más de dos rentas de garantía de ingresos y a los que ya estaban percibiendo la prestación se les dio el trámite de audiencia

los requisitos pero hay que tener en cuenta que en el registro entre otras cosas aparece el número máximo de plazas que puede tener

tiene que ver con un alojamiento en vitoria donde se habían solicitado sí señora garrido donde se habían solicitado ocho expedientes concedidos donde a las personas se les cobraba un alquiler de trescientos euros lanbide pagaba la pensión complementaria de vivienda de doscientos cincuenta y este alojamiento no estaba registrado

y además no se trataba de un caso de alojamiento temporal porque las personas que estaban alojadas en el mismo llevaban allí empadronadas desde el dos mil diecisiete es decir hace ya cuatro años por tanto estamos hablando de un caso concreto que no cumplía los requisitos y que además no se ha dado ni un solo caso ni en bizkaia ni en gipuzkoa ni tampoco está generalizado entonces a ver si centramos claramente cuál es el problema que estamos hablando y además me consta que para este caso concreto han estado

han estado con la viceconsejería de empleo para buscarle una solución a ese caso concreto pero no hablemos de una generalidad y de un problema

percepción de renta de garantía de ingresos para un colectivo que son las personas con enfermedad mental porque no estamos hablando en ningún caso de eso es por ello por lo que no vemos la necesidad de tener que modificar la actual normativa tenemos sobre la mesa el compromiso de proceder a la reforma de la renta

y recogido también en el acuerdo de gobierno entre los nacionalistas vascos y los socialistas vascos y además existe el compromiso de que

la reforma de la renta de garantía de ingresos para que pueda entrar dentro del parlamento vasco antes de

del año dos mil veintiuno se inició se intentó la reforma de la renta de garantía de ingresos en la anterior legislatura

no pudo llevarse a cabo hemos vuelto a retomar el compromiso en esta legislatura pero ahora nos hemos encontrado con que en el intermedio se ha producido una situación

a la hora de volver a mirar todo el proyecto de ley de la reforma de la renta de garantía de ingresos y no es otra cosa que la aprobación

de algo tan importante como el ingreso mínimo vital y esa aprobación del ingreso mínimo vital que se firma en septiembre del dos mil veinte se tiene que incorporar a este proyecto de ley de reforma de renta de garantía de ingresos

el tener que revisar muchas cuestiones como pueden ser referentes a unidades de convivencia como pueden ser muchas cosas

ese ingreso mínimo vital y no se puede recoger de una forma diferente para el ingreso mínimo vital

ese proyecto es un proyecto muy amplio y eso implica un trabajo muy concienzudo para poder hacer compatible y que se exija aunque tengan diferentes requisitos pero que los procedimientos conceptos generales no sean diferentes para el ingreso mínimo vital y para la renta

la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital por tanto nosotros no estamos con la necesidad de tener que reformar ahora la actual normativa de la renta de garantía de ingresos para un supuesto concreto que no cumplía

de otras vías sí que por supuesto estamos de acuerdo en la reforma de la renta de garantía de ingresos pero esta reforma tiene su proceso y se tendrá

a cabo y se cumplirá con el calendario legislativo y con el plazo marcado dentro del mismo es por eso por lo que nosotros no hemos firmado la enmienda transaccional que se ha firmado hoy entre el grupo

porque no estamos de acuerdo en la necesidad de tener que reformar la normativa actual en este caso

las prestaciones de personas con enfermedad mental que viven a día de hoy en viviendas comunitarias fuera de la red de diputación señora sánchez esto es así dicho por los trabajadores de lanbide y no niegue porque

viviendas comunitarias también por llamarlas de alguna manera porque en algunos casos no cumplen los requisitos

a personas que se han quedado fuera de la red pública de diputación por falta de plazas o sea que a ver de dónde viene el problema también aquí y

corresponde y que se adecúa a sus necesidades encima les vamos a quitar la única prestación con la que además pagan ese recurso en el que viven vamos pues no sé a quién se le ha ocurrido esta genialidad

señora sánchez más allá de los criterios que le haya podido pasar el departamento de la señora mendia yo le pediría una mayor sensibilidad con las personas con enfermedad mental no es un caso aislado y le pediría también que se acerque a esta realidad no es un caso aislado

por lo tanto no es un caso circunscrito a vitoria y si no infórmese pero no es un caso circunscrito a vitoria es que las personas con enfermedad mental

en los que intervienen varias instituciones porque necesitan asistencia social y sanitaria que el espacio

no asumiendo los gastos que le corresponden en las diputaciones forales no aprobando ese decreto de cartera de servicios sociosanitarios

absolutamente vulnerable en donde no les dan nada más en donde no les dan nada más y la única alternativa que tenían estas personas era cobrar

y con ese dinero sufragarse este tipo de viviendas es que era la única alternativa y ustedes ya les han dejado sin la única alternativa que tenían claro ya

no se estaba aplicando bien el decreto pero cómo me puede salir aquí y me dice que no se está aplicando un decreto que es el del año dos mil diez que ustedes que cuando quieren

con muchos puntos absolutamente farragosos y son incapaces de modificar un decreto para dar una solución a las personas que se han quedado en la calle

pero yo no sé si ustedes cuando hacen este tipo de argumentaciones

son incapaces de modificar un decreto para dar una solución a etas personas u otro tipo de solución

de plazas con este tipo de viviendas pero si hay soluciones mire cuando me decía que son casos aislados mire es que la lista y esto se lo digo también al señor tellería de las personas que están en lista de espera en álava

en álava son setenta y seis personas es que ustedes desde que gobierna la diputación foral de álava que es el caso que más conozco no se financia ninguna plaza de salud nueva no se ha financiado ninguna plaza de salud mental nueva

además sistemáticamente están diciendo no a propuestas de este grupo en relación a habilitar más recursos para este tipo de personas estas personas ahora están

y es de justicia y de dignidad y de solidaridad en una sociedad en la sociedad vasca cuyos dirigentes y cuyos responsables políticos que en este momento están gobernando darles una solución miren las mayorías absolutas

que ustedes tienen en este momento en muchas instituciones les valdrán para sacar votaciones

no tapan errores y no buscan soluciones a problemas

cuando me hablaban del decreto lo ha dicho la interviniente de la portavoz de bildu hoy ha habido

de su diputado hoy en las juntas generales de álava si ha mostrado su preocupación por este tema el señor sola que anteriormente además estuvo con la señora artolazabal sobre este tema en la diputación foral de álava

que están viendo las posibilidades de modificar el decreto cómo salen aquí y me dicen que el decreto no se puede modificar si están estudiándose las posibilidades en el gobierno vasco de modificar el decreto es que ustedes entre ellos ustedes no tienen interlocución entre las instituciones y entre su propio gobierno vasco yo no sé señora sánchez qué directrices le ha pasado la señora mendia

de cambiar este decreto en definitiva yo creo que obviamente

de este gobierno y en este momento de los partidos que están gobernando ustedes no se pueden predicar como el gobierno de las personas y luego abandonar a personas que en este momento se han quedado en la calle en situación de abandono en

de especial vulnerabilidad que son personas que están con una enfermedad mental que son personas que no tienen los recursos asistenciales que necesitarían por la inacción del gobierno vasco y de las diputaciones forales que ustedes gobiernan cambien el decreto concierten plazas busquen soluciones pero por favor

primero de los problemas el cuarto de los puntos de la enmienda transaccional se refiere a la falta

conveniadas para las personas con enfermedad mental nadie o por lo menos por parte de los grupos que sostienen al gobierno vasco ninguno se ha referido a esta cuestión que en realidad es el fundamento

que genera el problema hay

partiendo de ahí se genera un problema indirecto que es

a la vista de la falta de plazas es necesario que el tercer sector actúe y disponga de espacios para que las personas

tengan estos recursos habilitados para ellos y para ellas y en base a esta situación tan dramática que es la falta de financiación pública para estas personas

de esta circunstancia lo que se viene aquí a decir es que

interpretación restrictiva del decreto no cumplen los requisitos de accesos a la rgi en su defecto si sí tuviesen

el problema fundamental si sí la tuviesen se aplicaría esa excepcionalidad y recibirían la prestación por parte de lanbide y por tanto

no reconocer que es absurda la situación y que es de una

me parece sorprendente en fin aquí se han evidenciado cosas muy simples hay una falta de financiación respecto a plazas públicas ofertadas por la diputación y eso conlleva un problema que es la incapacidad de acceder a un recurso como es la rgi porque las personas que quieren acceder a este recurso

tutelados por el tercer sector y en este caso esto no está contemplado como una circunstancia que permita

el resumen de lo que se ha mencionado y si esto no es una disfunción ya me dirán ustedes qué es y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un derecho subjetivo como he mencionado en mi primera intervención que se pongan

o corsés a la percepción de una prestación que es un derecho subjetivo y que además esos corsés que se establezcan sean como los que se han mencionado aquí

en fin que estamos hablando de personas con enfermedad mental que al no tener plazas conveniadas se están yendo al tercer sector para que les

un recurso que no les brindan las instituciones y que a la vista de esa circunstancia no pueden percibir la rgi que

me parece muy preocupante y me parece preocupante en cuanto a la reforma de la rgi que vamos a tener que abordar en los próximos meses porque si esta es la dirección de los partidos que sostienen al gobierno vasco en relación con la reforma de la rgi

porque en un caso tan concreto que parece tan evidente y tan simple la opinión de los partidos que sostienen al gobierno vasco es esta pues ya me dirán ustedes respecto a las menciones que he hecho en mi primera consideración

respecto a los cambios que ya propusimos en la anterior legislatura y que no tuvieron a bien considerar

la referencia del salario mínimo interprofesional respecto a las subidas o eliminar la referencia a la empleabilidad

y considerar la naturaleza de derecho subjetivo en el caso de la rgi en fin

las referencias que se han hecho técnicas al cumplimiento del acuerdo que ya digo que en nuestra opinión es una interpretación restrictiva del mismo

no denotan una buena dirección para un acuerdo con nuestra formación política en relación con la modificación

llegado el momento cuando toque abordar esta cuestión más profusamente sea diferente

que hay otras cuestiones que hay que poner sobre la mesa como es la concertación del ingreso mínimo vital en relación con adecuación del mismo a la rgi bien pero

muy importante pero respecto a esto en fin y tampoco han hecho ningún tipo de mención al tercer punto

que no se ha cumplido relativa al compromiso que publicar los criterios de tramitación de la renta de garantía de ingresos

en fin esperemos que la dirección que adopten los partidos que sostienen al gobierno cambie y que en relación con esto la oportunidad

no voy a insistir en la cuestión de que esto no es un caso aislado porque ya lo han hecho

toda y evidentemente ustedes han hecho

para llegar al acuerdo de la enmienda transaccional la misma negociación técnica de negociación que han llevado a cabo

que hemos debatido anteriormente hoy aquí ustedes han redactado la enmienda entre ustedes y cuando estábamos

si nos gustaba al grupo nacionalista y a nosotros la enmienda transaccional a la que habían llegado ustedes y hombre

no es ninguna buena forma de negociación cuando se intenta realmente

era evidentemente no llegar al acuerdo por eso han utilizado esa técnica de negociación nosotros evidentemente sí que

hemos preguntado y lo hemos visto se trata y además así lo ha dicho hoy en unas declaraciones que ha hecho el diputado foral de bienestar social se trata de sí sí las he escuchado yo también eh se trata el problema tiene que ver con una calificación adecuada de esos alojamientos si tienen esa calificación o no tienen esta calificación si cumplen los requisitos o no cumplen los requisitos

para este caso concreto ya he dicho que se está reunido con ellos y se están viendo y buscando soluciones pero señora garrido señor soto tiene que ser necesariamente a lo mejor esa solución

a lo mejor la solución no está precisamente ahí porque creo que a lo mejor no es la vía más adecuada para buscar esa solución

en eso están intentando buscar la solución más adecuada pero no ponga y plantee esto como si fuera una generalización porque no lo ha sido han sido casos muy y es lo que ha habido y es a lo que se está buscando la solución y en ningún caso se trata y va dirigido a un colectivo concreto sino que se trataba de no cumplir los requisitos de esos alojamientos

esos alojamientos de carácter permanente y no de carácter temporal que es lo que marca el reglamento entonces

es por lo que han tenido el problema y ya he dicho la solución se está intentando buscar pero no generalicemos que se ha producido esa situación sobre ese colectivo

la realidad de lo que ha pasado entonces centremos correctamente la situación y evidentemente tenemos sobre la mesa la reforma de la renta de garantía de ingresos y como ha dicho

que cuando entre el proyecto de ley con las modificaciones que se tienen que realizar necesariamente para incluir dentro del mismo todo lo que conlleva

a cuando se redactó todo ese proyecto de ley y que necesariamente conlleva ahora mismo el tener que retocar muchas cosas para que se produzca esa coordinación entre la inclusión del ingreso mínimo vital y todo el proyecto

de la anterior legislatura pues se hará se cumplirá con el calendario legislativo está previsto para finales de este año se tiene que hacer toda esta modificación

no es baladí es bastante importante lo que conlleva

vital porque conlleva tocar muchas cosas para que vayan en coordinación

para lo que se pida para la renta de garantía de ingresos etcétera etcétera etcétera no me voy a extender ahora esa cuestión porque no es la cuestión de fondo hoy aquí y espero desde luego en ese momento cuando tengamos que

y en este parlamento la reforma de la renta de garantía de ingresos que los diferentes grupos aporten

el mayor consenso posible si realmente en esta legislatura los grupos de la oposición quieren llegar al acuerdo en este tema cosa que no hicieron en la anterior

en su primera intervención decía usted que el convenio sociosanitario no cumple con álava

al parecer con gipuzkoa y bizkaia sí mire yo no suelo aceptar ese tipo de argumentaciones puede que álava tenga sus necesidades puede que sea todo mejorable

de diferencia de distancia que se puede hacer entre álava

de su argumento pero quería dejarlo claro porque hay veces que se hace cierta distinción se suele querer hacer en algunos discursos cierta distinción o distinciones territoriales pero mire me ha dado usted una buena noticia y me voy más tranquilo no sabía que el señor sola había hecho esas declaraciones pero si las ha hecho

y además va a tomar el problema me deja más tranquilo me deja bastante más tranquilo y además vienen bien con lo que le he dicho porque le he dicho

aquí la responsabilidad de la diputación foral de álava

y si el señor sola está preocupado no tardará en estar ocupado en tercer lugar ha hablado usted en su primera intervención de un acuerdo el intento de un acuerdo hombre a mí me ha gustado antes

que reconoce que ha habido un intento pero no intención no he visto intención no he visto intención

reconozco que ha habido un intento y decía usted que para estos casos está la rgi sí sí para estos casos sí puede estar la rgi sí pero reconocerá usted que probablemente

que tiene este colectivo no puede esperar a que nosotros

la legislatura pasada señor soto oiga de verdad

no me hable de diferencias entre la rgi o

está ha salido ahora todo el tema del ingreso mínimo vital y realmente

con todos sus problemas del sistema no no me haga así ustedes están

bien por lo tanto si quiere cuando llegue nos sentamos y comparamos si las sensibilidades sociales están en ello

se tienen que apoyar en el tercer sector el tercer sector en euskadi es maravilloso pero le voy a decir una cosa en esa imv todo prácticamente

todo o prácticamente todo o gran parte se deja al tercer sector por lo tanto no le acepto lecciones de ningún tipo en ese sentido

tienen un no sé qué orden encima de la mesa para que estos no entren eta horrelako

eurek esanda tenemos una orden para revisar estos expedientes y en su caso restringir

una pregunta concreta señora sánchez para aquellas personas que están fuera de los recursos de diputación para aquellas personas que están atendidas por el tercer sector porque

qué hacemos con estas personas la pregunta concreta a un problema concreto y ustedes